el próximo veintinueve de marzo es la fecha señalada para el brexit y en su caso se producirá la subsiguiente redefinición del proyecto europeo en momentos de incertidumbre y cambio la unión europea está encontrando serias dificultades para ofrecer respuestas y soluciones propias retos globales hemos conocido dificultades en el ámbito económico

dificultades en la acogida a personas migrantes o que buscan refugio

para incorporar al empleo a los colectivos con mayores dificultades y para la sostenibilidad del sistema de bienestar dificultades en el ámbito político e institucional

a las aspiraciones legítimas de naciones sin estado que quieren ser y formar parte de europa el debate sobre el futuro de la unión está abierto

firme y está acreditada en el documento visión de futuro de europa que hemos aportado para propiciar una mayor integración y participación en este proyecto común

en el ámbito económico se mantiene la tendencia al crecimiento las perspectivas siguen siendo positivas para la económica y también para la generación de empleo pero el clico económico se acerca a un punto de madurez

y la previsible tendencia al alza del precio del dinero también por la necesidad creciente de garantizar las bases del sistema de bienestar

en este sentido han cobrado especial relevancia las demandas de las personas pensionistas

no van a ser suficientes para garantizar el sistema de pensiones por lo que sí o sí habrá que plantear soluciones de futuro con realismo y responsabilidad el pacto de toledo es el escenario para compartir el diagnóstico y adoptar las decisiones estratégicas

el objetivo económico y social fundamental de esta legislatura en euskadi es lograr que la tasa de paro se sitúe por debajo del diez por ciento

y hoy adelantamos la posibilidad cierta de alcanzarlo el próximo año no es suficiente porque nuestro objetivo es crear empleo

en todo caso incluso en condiciones de incertidumbre política social y comercial la tendencia económica en euskadi puede seguir siendo favorable

esta es la hoja de ruta que conduce la política económica del gobierno vasco durante este periodo

político destaco dos cuestiones relevantes el nuevo gobierno español y la evolución política en cataluña el gobierno que presido

la disposición al diálogo institucional y el acuerdo bilateral presentamos al anterior gobierno español iniciativas en todos los ámbitos economía

autogobierno paz y convivencia es cierto que alcanzamos acuerdos relevantes

el concierto económico y el cupo también los avances en la junta de seguridad y la aprobación de las inversiones para el tren de alta velocidad reconozco su importancia pero nos habría gustado una mayor disposición al diálogo institucional y político y que las relaciones entre las instituciones vascas y del estado

al pacto estatutario este parlamento ha reprochado al gobierno español la dinámica constante de recursos a las leyes aquí aprobadas

no ha sido efectivo no se ha demostrado sensibilidad real para cumplir el estatuto ni para preservar su espíritu ni para completar el autogobierno

confío en que las diversas estructuras del estado demuestren una mayor sensibilidad

y la singularidad de nuestro autogobierno confío en una mayor disposición al diálogo con voluntad de acuerdo cataluña vive una situación de permanente bloqueo político e institucional

en procesos de distensión distensión y diálogo un diálogo con vocación y voluntad real de acuerdo en este marco abogo

al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el procés y se encuentran presas la prisión provisional

la judicialización de la política es contraproducente creo en la acción política corresponde a la representación política de la sociedad

para ofrecerse soluciones en el escenario político vasco me detengo en una cuestión nuclear

el estatuto de gernika es el acuerdo de convivencia del que nos dotamos hace treinta y nueve años es inaceptable que ese pacto

siga hoy sin ser cumplido en su integridad el gobierno vasco trabaja para que se cumpla plenamente así lo defendemos y exigimos nuestro compromiso es contribuir a generar el clima que favorezca un avance efectivo

nos une la convicción de que este es el espacio y el tiempo para actualizar el autogobierno reconocido ampliarlo y profundizar en sus potencialidades a través de una propuesta institucional consensuada pactada

que cuente con garantías de cumplimiento efectivo en ambos casos el nuevo gobierno español tiene la oportunidad de comprometerse realmente a través de la escucha activa y el diálogo constructivo con las instituciones vascas

centro la mirada en nuestro propio gobierno cabe decir que el gobierno vasco es previsible sí sin problema porque seguimos trabajando en el cumplimiento del programa y de los objetivos de esta legislatura cumplir los compromisos es una inversión en confianza

siempre a generar un clima político de confianza favoreciendo el diálogo y el acuerdo así lo he hecho durante estos seis años y también lo hago ahora en relación a un instrumento fundamental como es el presupuesto es la herramienta básica para seguir ajustando debidamente la práctica de las políticas públicas a los paramentos de disciplina económica de la unión europea

para generar empleo y garantizar las políticas sociales objetivos

la sociedad quiere disfrutar de este nuevo tiempo un tiempo en el que queda atrás la violencia de eta un tiempo para avanzar desde el diálogo y el acuerdo político para seguir superando la parte más dura de la crisis económica comparto este anhelo de la sociedad vasca es tiempo de construir juntos un nuevo futuro comparto también el anhelo por la igualdad

euskadi quiere contribuir a profundizar en la igualdad de oportunidades de derechos igualdad plena en lo social

la justicia además de reflejo de la sociedad a la que sirve debe ser instrumento para construir la sociedad a la que aspiramos hoy recordamos a todas y cada una de las mujeres que sufren ataques acosos intimidaciones recortes de sus derechos y libertades

el convenio de estambul establece un vínculo indisoluble entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres la respuesta que estamos valorando es

de esta forma profundizando en los cimientos de la actual ley

y lucha contra la violencia contra las mujeres las leyes tienen también una función pedagógica el mensaje es a mayor igualdad menor espacio para la violencia contra las mujeres no soy autocomplaciente porque nuestro referente son países y sociedades más avanzadas de europa

de construir un futuro en igualdad real y efectiva hasta aquí una primera visión o esta primera parte de visión

consciente de que sigue siendo necesario colaborar y sumar para responder a los retos que afrontamos gobernuaren jarduna

objetivo uno decíamos alcanzar el ciento veinticinco por ciento del producto interior bruto per cápita de la unión europea

y tiene gran peso en el índice de desarrollo humano pues bien hoy euskadi se sitúa en el ciento veintidós por ciento de la media de la unión europea en paridad de poder adquisitivo el producto interior bruto per cápita es de treinta y tres mil euros en euskadi

la pujanza del sector industrial es fundamental para mejorar nuestra renta per cápita y alcanzar el veinticinco por ciento del valor añadido bruto industrial es un objetivo básico

euskadi alcanzó el veinticuatro coma dos por ciento en dos mil diecisiete una décima más que en el año anterior dos mil dieciséis objetivo dos

la tendencia es positiva la tasa de paro se ha reducido tres coma tres puntos desde el comienzo de la legislatura en dos mil dieciséis estaba en el trece coma cuatro por ciento y hoy en el diez coma uno por ciento crece la afiliación a la seguridad social estimamos la creación de diecisiete mil ochocientos empleos netos este año

la tasa de paro se puede situar por debajo del diez por ciento un año antes de lo anunciado o de lo estimado en modo alguno nos podemos confiar y menos conformar

reducir el paro lo máximo posible y además mejorar la calidad del empleo objetivo tres decíamos

pudiesen tener una primera experiencia laboral en dos mil diecisiete

la tasa de paro entre la juventud ha descendido por debajo del quince por ciento ahora bien

la apuesta por la juventud objetivo cuatro poner en marcha cien proyectos estratégicos de innovación

hemos invertido cuarenta y tres millónes de euros en treinta y cinco proyectos estratégicos aprobado el plan estratégico de la red de parques tecnológicos

en pequeñas y medianas empresas objetivo cinco decíamos

del veinte por ciento de emisión de gases de efecto invernadero este indicador

dos mil veinte toma como referencia el año dos mil cinco euskadi en base al último dato de eurostat de marzo de dos mil diecisiete

se han reducido las emisiones un veintiséis por ciento y la reducción media en la unión europea es de un diecisiete coma tres por ciento objetivo seis decíamos también cumplimiento del compromiso europeo de déficit público en dos mil diecisiete cumplimos el objetivo de hecho cerramos el ejercicio con superávit como resultado de una gestión responsable el aumento de la recaudación y el acuerdo de liquidación de los cupos

nuestro compromiso es garantizar el desarrollo y la cohesión social sin hipotecar a las generaciones futuras

la prioridad social desde comienzo de la legislatura el presupuesto en educación salud y protección social se ha incrementado en cuatrocientos tres millónes en dos mil dieciséis el gasto social fue

en la propuesta presupuestaria para dos mil diecinueve el gasto social superará por primera vez

y también relativos representaba el sesenta y cuatro coma nueve por ciento del presupuesto en dos mil dieciséis y asciende al sesenta y siete coma tres por ciento

objetivo quince autogobierno y nuevo estatus político para euskadi en relación al autogobierno me centro en presentar las actuaciones propias del gobierno vasco consecución de los acuerdos para la aprobación de las leyes del cupo y del concierto económico

traslado al gobierno español del mandato del parlamento vasco para que presente en seis meses

puesta en marcha de la comisión bilateral de cooperación entre la administración del estado y la administración de euskadi para el traspaso de las treinta y siete transferencias pendientes

al acto organizado el veintiocho de febrero con motivo del ciento cuarenta aniversario del concierto económico vasco

el concierto concita el respaldo unánime de las instituciones vascas y representa

el elemento esencial del compromiso político de convivencia con el estado la institución del concierto pacto bilateral y núcleo central del autogobierno vasco es una referencia útil como modelo de convivencia institucional

y garantía de bienestar para la sociedad una referencia necesaria para avanzar en un nuevo acuerdo pacto de autogobierno para el futuro de euskadi

como cierre de esta segunda parte centrada en presentar las principales realizaciones del gobierno vasco durante este año

exterior e internacional documento o visión de futuro de europa nuestra aportación al debate abierto sobre el futuro de la unión presentación high level political forum de naciones unidas por primera vez

firma de memorandos de entendimiento con quebec y gales que se incorporan a la red de socios estratégicos de euskadi

participación de encuentros internacionales entre los que destaca el congreso de formación profesional la reunión de la organización mundial de turismo la

o el encuentro deep learning centrado en la ciencia y tecnología

para la institucionalización de la figura de región asociada gure gobernu ekintzak berezkoa du europara eta nazioartera begiratzea

cierro este apartado de iniciativas en el eje de crecimiento sostenible con un doble compromiso con la inversión y la innovación

hoy adelanto la intención del gobierno vasco de priorizar el incremento de la inversión propia un siete por ciento en la propuesta presupuestaria para el próximo año vamos a impulsar un programa específico de inversiones productivas inversiones en proyectos de innovación y crecimiento económico

y salud más inversiones para generar riqueza y empleo de calidad para garantizar las políticas sociales y el sistema vasco de bienestar

la innovación constituye la palanca para que las empresas ganen competitividad

de la inteligencia artificial y sus aplicaciones no podemos perder el tren nuestro compromiso es impulsar en colaboración con empresas y centros tecnológicos treinta y cinco proyectos estratégicos tractores del sistema científico tecnológico vasco

vamos a incentivar los proyectos de investigación tecnológica en nuestro tejido industrial

recuperen el esfuerzo inversor mermado durante la crisis este doble compromiso público tendrá su reflejo en un incremento del siete por ciento en inversiones propias y del cinco por ciento en investigación y desarrollo en el prepuesto dos mil diecinueve

de desarrollo humano en políticas sociales nos proponemos alcanzar un amplio consenso en la nueva ley de garantía de ingresos y para la inclusión social

vamos a actualizar el decreto regulador de los centros asistenciales para personas mayores se iniciará la tramitación a través de sareen sarea

de euskadi aprobaremos un nuevo decreto por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad

para situar nuestro sistema en una posición de referencia europea aprobaremos el plan de infraestructuras educativas dos mil diecinueve dos mil veintidós avanzaremos en la estrategia de digitalización de la escuela pública pondremos en marcha los planes para el desarrollo de una escuela inclusiva y de coeducación y prevención de la violencia de género este año abrirá sus puertas el nuevo hospital de eibar aprobaremos la estrategia para la atención primaria y la vinculación de onkologikoa

de cribado de cáncer de cérvix en araba que se extenderá a todo euskadi en dos mil diecinueve

nuestros objetivos son impulsar la internacionalización de la cultura vasca atraer nuevos públicos a eventos culturales y fomentar la participación de las mujeres en la cultura subrayo la creciente actividad del instituto etxepare y el impulso del uso del euskara en la vida cotidiana a través de la iniciativa euskaraldia

aspiramos también a suscribir un marco de colaboración estratégica con la nueva institución de iparralde y seguir reforzando la colaboración con la comunidad foral de navarra

en acción exterior trabajamos para incorporar la adhesión del conjunto de instituciones vascas al compromiso de la agenda dos mil treinta

con el objetivo de poner en valor la contribución de distintos agentes y sectores a nuestra proyección exterior así como reforzar el concepto

electrónica de justicia pretendemos la apertura de dos nuevos puntos de encuentro familiar por derivación judicial en tolosaldea y lea artibai nuestra voluntad es aprobar este año el decreto que institucionalice la mesa de diálogo social

tal y como resolvió el pleno del parlamento vasco en relación a la seguridad estamos procediendo a la renovación del parque móvil de la ertzaintza y la adecuación de las ertzainetxeak al nuevo modelo policial de proximidad

incorporando a la academia setecientos ochenta agentes

de policías locales y desarrollaremos la nueva aplicación para mujeres amenazadas en el ámbito de igualdad estamos desarrollando una iniciativa de especial relevancia a la estrategia contra la brecha salarial dos mil treinta

nuestro objetivo es reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres

y sesenta medidas de actuación así por ejemplo

incentivar la conciliación corresponsable equiparar permisos de paternidad y maternidad hasta las dieciséis semanas

o programas dirigidos a la promoción de las mujeres en las empresas la igualdad es una inversión en convivencia

justamente ocupar el lugar que le corresponde en el ámbito familiar político económico y social

hemos avanzado estoy convencido de que euskadi será un país más justo socialmente más cohesionado y económicamente más competitivo si juntos

respondemos al reto de la igualdad efectiva y real nuestro objetivo es situar a euskadi

y en la lucha contra la discriminación laboral hasta aquí las principales iniciativas en crecimiento sostenible y desarrollo humano

presento a continuación las prioridades en materia de convivencia y derechos humanos comparto dos criterios rectores primero

segundo invertir en sociedad promover una cultura de convivencia asentada en bases éticas que constituyen voluntades sociales mayoritarias

la atención a las víctimas es una prioridad vamos a profundizar en los ámbitos de diálogo cooperación y acuerdo con las víctimas del terrorismo y la violencia

en clave de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por la violencia y de modificación de la política penitenciaria

poner en marcha la ley de reconocimiento y reparación de victimas de vulneraciones de derechos humanos iniciativas para responder a los retos emergentes de la convivencia

ley de centros de culto consejo interreligioso vasco programa de actuación para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca

y desarrollar las iniciativas del cuarto plan director dos mil dieciocho dos mil veintiuno de cooperación para el desarrollo

de políticas termino este apartado con una reflexión de carácter estratégico los discursos que pretenden desvalorizar los derechos humanos se extienden hoy sin dejar de atender lo pendiente

responder a los nuevos retos nuestra prioridad es afrontar y acertar en los nuevos retos de la igualdad la convivencia plural

o las migraciones euskadi ha sido históricamente un territorio de emigración y de inmigración la emigración

y la inmigración nos ha enriquecido como pueblo

nos enriquecen con su cultura y aportan capacidad de trabajo a nuestra economía planteo un pacto social vasco para la migración

estamos desarrollando una respuesta integral con iniciativas en los ámbitos europeo estatal

somos conscientes de que las sociedades con mayor índice de equilibrio social son las más prósperas los países con más capacidad de acogida

y mejor convivencia entre diferentes son los más desarrollados auzolana da gure eredua elkarrekin lan egiten badugu

irtenbide bat emango litzaioke estatua bera nahigabetzen duen lurralde krisiari me refiero al gobierno español y la necesidad de afrontar esta etapa con altura de miras tras casi cuarenta años no se cumple el estatuto

y no se asume la realidad plurinacional del estado si se mantiene esta cerrazón este doble no cuál es la alternativa

que pueden conducir a decepciones y frustraciones que nunca sabemos dónde acaban por una nueva actitud que genere ilusión y desemboque en una realidad de pacto y convivencia emplazo al gobierno español a un doble sí

nuestro autogobierno reconocido y asumir la realidad plurinacional del estado es tiempo de poner en valor y cumplir el pacto alcanzado en el pasado

con hechos que merece la pena apostar por la concordia y la convivencia más acuerdo significa mejor pacto

durante meses cinco formaciones distintas en tradición trayectoria y experiencia

un diagnóstico y una visión de futuro en el seno de la ponencia de autogobierno la ponencia ha trabajado en pos del acuerdo y esa orientación debe mantenerse

hoy me van a permitir invitarles a acariciar ese acuerdo

me sitúo ante mi responsabilidad como lehendakari y también ante mi responsabilidad cívica y social similar a la de cualquier otra persona en este país

mi primer deber es proteger y lograr que se cumpla el autogobierno reconocido la tendencia en ocasiones es

e incluso ignorar lo conseguido hoy sin embargo en un mundo incierto y competitivo somos más conscientes de que hemos heredado un autogobierno que nos permite si lo cuidamos mantenernos

consciente de las limitaciones y del transcurso del tiempo tengo en la más alta valoración lo que somos y lo que hemos construido con nuestro autogobierno

lo que tenemos y compartir los cambios que necesitamos necesitamos crecer desde el acuerdo y el acuerdo se sustancia aquí

imaginemos hoy el escenario de un amplio acuerdo es positivo es posible el acuerdo es positivo porque supone reconciliar clarificar avanzar garantizar supone crecer

profundizando en los nexos que revela el propio trabajo de la ponencia adecuar el autogobierno a la nueva realidad de la convivencia

profundizar en la pluralidad y el reconocimiento de los distintos sentimientos de pertenencia garantizar los derechos y políticas sociales primar la cohesión y la justicia social actualizar el catálogo de competencias y ampliar el fondo competencial

asentar la vocación europea y la proyección internacional de nuestro país estos nexos pueden y deben facilitar la convergencia

avancemos en un escenario para el acuerdo el concepto troncal de nuestro programa es el autogobierno efectivo y garantizado

la actualización de los derechos históricos puede establecer un mecanismo que obligue a las instituciones vascas y del estado

nuestro referente europa es un ejemplo en su funcionamiento de democracia plurinacional el marco para la convivencia armónica de realidades nacionales diversas en europa encontramos ejemplos de respuesta positiva a contenciosos de carácter territorial

escocia gran bretaña como ejemplo de cultura política para reconocer la realidad plurinacional y aplicar el principio democrático de manera pactada

anclado en el reconocimiento de la identidad nacional flamenca y valona que se expresa en la capacidad de representación conjunta ante las instituciones europeas

suiza con un modelo de soberanía compartida el respeto a la bilateralidad y el ejercicio de la democracia directa

así como la lealtad multilateral federal el modelo confederal funciona para dar solución a realidades en las que conviven diferentes sentimientos de pertenencia nacional

euskadi también se organiza internamente en base a un modelo que asume su propia diversidad y pluralidad la foralidad tiene un sentido esencialmente confederal este modelo funciona por qué no aplicarlo en el estado

es posible una relectura más ambiciosa de la disposición adicional primera de la constitución y de la disposición derogatoria que considera definitivamente derogada la ley de abolición foral de veinticinco de octubre de mil ochocientos treinta y nueve

completada en mil ochocientos setenta y seis supuso el cuestionamiento de nuestros derechos históricos y la consagración de la unidad impuesta

la disposición adicional y la derogatoria de la constitución de mil novecientos setenta y ocho contienen de manera implícita un potencial que no ha sido desarrollado en plenitud

la actualización de nuestros derechos históricos puede propiciar el pleno reconocimiento de la personalidad política de nuestro pueblo y un conjunto de poderes singular

que permita el desarrollo de las aspiraciones colectivas avancemos en un escenario para el acuerdo un acuerdo es más

la grandeza de la democracia no se conforma con reflejar el derecho de la mayoría suma también la consideración a la minoría con el propósito de facilitar la integración

un acuerdo mayoritario en una norma básica de convivencia garantiza su futuro garantiza su futuro

la clave es ensanchar el acuerdo más acuerdo significa mejor pacto el objetivo de esta nueva etapa sería la asunción de euskadi como realidad nacional con voluntad histórica de autogobierno y de decisión y la consideración del estatuto

de ambas cuestiones derivan consecuencias jurídicas políticas y relacionales

y de auto organización institucional singular una relación con el estado basada en la bilateralidad y el pacto y un sistema de garantías eficaz que impida la vulneración del autogobierno sobre esta base el nuevo estatus político de euskadi debe nacer con la ambición de responder